helburu eta ondorio garrantzitsuenak la grave crisis económica que padecemos ha incrementado el número de personas que no pueden hacer frente a las hipotecas sobre sus viviendas y en consecuencia

que termina con un desahucio el grupo nacionalistas vascos

máxime cuando hay menores involucrados además los desahucios ponen en serio riesgo de exclusión social a los y las afectadas siendo este uno de los problemas que más preocupa a la sociedad vasca es importante recordar que la modificación de la ley hipotecaria es competencia única

y aunque han dado algún paso al respecto es escaso e insuficiente para todos los grupos del arco parlamentario salvo el partido popular que con su mayoría absoluta está haciendo oídos sordos a las directrices marcadas por europa a los grupos de la oposición lo que es peor si cabe a la sociedad que está clamando por un cambio de la obsoleta e injusta ley hipotecaria bestalde esan beharra dago

beti egongo da prest akordioetara heltzeko por todo ello le preguntamos al consejero de administración pública y justicia que explique cuáles serán los principales objetivos y efectos del protocolo entre el gobierno vasco y el consejo general del poder judicial

la solución definitiva a este problema solo puede venir de la mano de una reforma profunda de la legislación hipotecaria

no está hoy por hoy en manos de este parlamento y las cortes generales al menos con su composición actual no parecen dispuestas a afrontar el problema en los términos en los que resultaría preciso hacerlo para atajarlo de raíz

obligadas a arbitrar fórmulas para paliar el daño que la legislación hipotecaria todavía vigente está haciendo posible a los colectivos más vulnerables a falta de soluciones legislativas que serían las definitivas se imponen es inevitable las paliativas el gobierno vasco ofrece ya a lo afectados por esta situación un conjunto amplio de prestaciones como el de

ayudas de emergencia social parque de viviendas etcétera pero se puede hacer más se puede hacer más porque estamos hablando de seres humanos desvalidos y es en ese contexto

se trata de un protocolo de colaboración que va a ser suscrito entre el consejo general del poder judicial el gobierno vasco y eudel con el objeto de facilitar a los servicios públicos de base el conocimiento

de los ciudadanos sin recursos el nivel municipal es como se sabe el más cercano al ciudadano y en consecuencia es también el idóneo para detectar los casos de vulnerabilidad y en su caso tramitar

las medidas más adecuadas para atender a las diferentes situaciones que pueden plantearse en un desahucio hipotecario la mayor parte de las veces la identificación por los servicios sociales de una situación de exclusión social o de especial vulnerabilidad se produce a instancias del propio

pero también existen supuestos en los que las personas afectadas no comunican a nadie su situación hasta que esta resulta ya irreversible son los efectos inevitables de la estigmatización social de la pobreza

como son los órganos judiciales los que conocen de primera mano

el protocolo les compromete a poner esta información en poder de los servicios sociales de base para que estos actúen de inmediato y puedan así atender a los afectados la comunicación temprana de los jueces y tribunales de una situación de riesgo de pérdida de vivienda permite

por sí mismos ayuda a las instituciones tengan la oportunidad de conocer y en su caso utilizar

más dramáticos del desahucio el protocolo será una más de las herramientas que utilice este gobierno para atajar este problema y si la tramitación se desarrolla con normalidad el protocolo podrá ser suscrito

es cierto por lo tanto señor arzuaga que he realizado este planteamiento al presidente del gobierno español lo he hecho porque comparto la visión de la sociedad vasca

que estima que la adaptación de la aplicación de la política penitenciaria es un recurso necesario en la actualidad soy consciente también de la realidad social

y por eso he planteado mi propuesta con las tres premisas de viabilidad que he contestado considero que preservar estas premisas de viabilidad es un objetivo fundamental eskerrik asko

me refiero a aquella comparecencia porque además de la cerrazón encontrada en madrid usted también parecía poner algunas dificultades a algo que se antoja realmente simple algo tan sencillo como el ejercicio de derechos fundamentales de las personas presas algo tan básico como la mera aplicación de la ley

la ley común la ley que debería ser igual para todos puede traer grandes avances en el ámbito penitenciario pero usted embarró esos pasos factibles con

ya que en aquel foro habló del presunto secuestro al que se somete a los presos por parte de su propio colectivo habló de la necesidad de arrepentimiento habló del reconocimiento del dolor causado condiciones requisitos estipulaciones para poder ejercer derechos para que se pueda cumplir la ley

se enrocará en lo complicado para dificultar que se responda a lo sencillo

se percibe debe ser sin presos políticos pero establecer condiciones no hace desde nuestro punto de vista sino dificultar ese terreno y que se puedan avanzar en cuestiones urgentes tales como la repatriación o el acceso de la libertad de quienes cumplan las condiciones para ello son pasos

de una voluntad de acatar y aplicar la ley

concreto próximo de cómo en madrid pueden interpretar esas exigencias de arrepentimiento y reconocimiento del dolor causado un caso que conocimos ayer mismo

xabier moreno son pareja siempre han estado en la misma cárcel

la última en villabona en asturias olga está a punto de ser madre

que daría a luz en el hospital de oviedo y que luego sería trasladada a otro centro

junto con su hijo y con su compañero xabier aún en estado olga ha sufrido amenazas por parte de funcionarios de prisiones con que

al bebe en villabona mientras ella sería llevada a otro centro fue chantajeada con separarla de su hijo y de su compañero a menos que firmase un documento desmarcándose del colectivo de presos políticos vascos es esta la situación

en que españa sustancia sus demandas señor urkullu de arrepentimiento y de reconocimiento del dolor causado

el chantaje más inhumano es así como interpreta la liberación del secuestro al que usted dice están sometidos

manifestado en la primera respuesta

en legislaturas anteriores y resoluciones también de gobiernos vascos anteriores

y estamos hablando también de lo que es las propias condiciones requisitos que el propio marco legal contempla tras cincuenta años el cese de la violencia de eta nos sitúa ante la oportunidad histórica de la paz

incidencia directa en el objetivo democrático de la normalización social de la convivencia adaptar la aplicación de la política penitenciaria al nuevo contexto que vivimos es un recurso necesario para contribuir a una política global de convivencia y en mi propuesta he planteado un doble objetivo por una parte promover la finalidad resocializadora

y el reconocimiento del daño causado que es absolutamente necesario me va a permitir tratar este tema con la máxima cautela porque todos sabemos que la política penitenciaria es materia delicada y sensible y por eso he tratado de situarme en la realidad y plantear las condiciones de viabilidad que deben tenerse en cuenta

el necesario avance a través de consensos progresivos creo que es necesario también atender a lo que es la realidad social y también la asunción de responsabilidad por parte de todos

lo que el gobierno vasco y el lehendakari han hecho con esta propuesta ha sido asumir la responsabilidad de estudiar e impulsar las posibilidades de acuerdo en esta materia con el gobierno español en función de esos objetivo y de esas premisas con el gobierno español que es quien ostenta la competencia

he expuesto los principios y los parámetros en los que ha sido planteada la propuesta

gracias presidenta señor lehendakari en el pleno de investidura usted dijo textualmente son momentos de invertir en las personas
y así vamos a centrar el esfuerzo en las inversiones de carácter social en equipamientos vinculados a la sanidad y los servicios sociales

y en este sentido vamos a invertir en nuestro mejor activo en el capital humano en educación y en conocimiento son promesas de su sesión de investidura que usted desmintió con un proyecto de presupuestos que se basaba en lo contrario en unos fortísimos recortes sociales

o la práctica eliminación del programa eskola dos punto cero o la paralización de infraestructuras sanitarias públicas previstas aunque no estuvieran empezadas

que ustedes trataban de favorecer la concertación con los centros privados y la progresiva privatización de la sanidad pública vasca o el tajo brutal que aplicaron a las políticas de innovación que venían del anterior gobierno o el cincuenta por ciento de recorte en la formación del profesorado

en la formación del profesorado de inglés todo lo cual sinceramente dice muy poco

por invertir en sanidad en educación en capital humano y en conocimiento creo que por suerte para la sociedad vasca ese proyecto de presupuestos ya es historia y hoy lehendakari la prórroga presupuestaria le ofrece a usted la oportunidad de cumplir con su palabra

dicho de otro modo está dispuesto el señor lehendakari a abandonar las políticas de recorte y austeridad a ultranza que se deducían del anterior presupuesto o sigue pensando
que son las únicas posibles para el actual momento que vive el país eskerrik asko

berretsi egiten du son momentos de invertir en las personas y para las personas

y así lo vamos a hacer señor pastor este gobierno presentó un proyecto de presupuestos dirigido a las personas por mucho que usted se empeñe en decir lo contrario dirigido a las personas

el más social de la historia de este país nunca antes un gobierno había presentado un presupuesto con el setenta y tres coma nueve por ciento de sus recursos destinados a empleo público y gasto social señor pastor sí

que gobernar es elegir hemos elegido a las personas esta es una decisión política y de calado primero las personas y primero los servicios públicos esenciales para las personas no hemos cerrado aulas en los colegios ni cancelado camas en los hospitales como ustedes auguraban señor pastor se mantiene la educación como servicio público y universal se mantiene la sanidad pública y universal

se mantiene el empleo público para garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía me puede usted citar usted señor pastor alguna comunidad autónoma española incluidas

en las que se hayan mantenido los servicios públicos como en euskadi eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna pastor jauna zurea da hitza

a la labor del anterior gobierno que le permite usted presumir de que no se han cerrado aulas ni camas de hospital porque eso fue un esfuerzo que desarrollo hasta el último minuto el gobierno socialista que le precedió en cualquier caso yo pensaba que usted además de testar de contestar con generalidades que no responden a mi pregunta

que el presupuesto que usted presentó era el más social de la historia cuando

setecientos once correspondían precisamente a un tajo en el gasto social el problema es que usted sigue pensando que hace lo correcto y me parece legítimo y que todos los demás no pensamos en otra cosa que en acosar y desgastar a su gobierno

para desgastar un gobierno que ya lo hace perfectamente por sí solo y ya que no nos hace caso a nosotros yo le pediré que haga caso

al señor esteban que le ha pedido expresamente al gobierno de españa que las medidas de recorte y usted dirá que se están imponiendo en todo europa y en españa en particular

y esa advertencia del señor esteban señor urkullu creo que vale también para usted porque explica el fracaso

el fracaso de un proyecto que aunque usted nos quiera vender lo contrario era un proyecto de recortes y de austeridad

a lo que dicen sus compañeros en madrid y se aplique el cuento eskerrik asko

los recortes que empezaron con el tiempo de rodríguez zapatero como presidente del gobierno español o con el lehenedakari patxi lópez en la legislatura anterior aplicando los recortes del señor rodríguez zapatero no se lo voy a recordar en todo caso señor pastor

en junio del año pasado ustedes optaron por lo más fácil no tomar ni una sola decisión que pudiera comprometer sus resultados electorales de octubre

este gobierno ha hecho lo que ustedes no hicieron durante tres años ajustar los gastos a los ingresos

y mientras lo hacían mientras lo hacían cambiaron ustedes su partido también cambió la constitución para que nadie más pueda hacer lo que ustedes hicieron saltarse a la torera el límite de déficit ustedes señor pastor

ustedes señor pastor limitaron la capacidad de gasto de este gobierno

están exigiendo a los demás y sin el más mínimo rubor todo lo que no quisieron no pudieron o no supieron hacer mire señor pastor este gobierno además

y si se confirma la flexibilización del límite de déficit se sumarán otros doscientos cuarenta y cinco millónes más compartidos en su destino

son medidas directas de estímulo a la reactivación económica de solidaridad con el empleo que ustedes no pusieron en marcha señor pastor este gobierno ha sido claro

ustedes hablaron y hablaron pero no hicieron señor pastor no pida a los demás que hagan en tres meses y medio lo que ustedes han sido incapaces de hacer en tres años y medio y dijeron que harían para comprometer al siguiente gobierno aun así proponemos también un plan renove del que luego hablaremos

eskerrik asko presidente andrea señor lehendakari en su plan de gobierno presentado en esta cámara la pasada semana dedica un capítulo entero

estatus político a una proposición

independiente previo referéndum al que usted llama

este tipo de iniciativas de soberanía de autodeterminación son de sobra conocidas en esta

en alguna otra ocasión lo que falta ahora es que se empiecen a conocer los extremos

con su plan por eso le solicito que explique abiertamente las diferencias o similitudes que tiene su nuevo estatus político para euskadi con la propuesta de estatuto político a la comunidad de euskadi llamada plan ibarretxe que se parece hasta en el nombre eskerrik asko

de plan ibarretxe a nuevo estatus político no sé en qué se parece

le agradezco que usted haga la referencia a que el planteamiento en el programa de gobierno

no se pierda señor basagoiti en calificativos o en denominaciones

la sociedad vasca aprobó un estatuto para euskadi este mismo parlamento aprobó por mayoría absoluta

en su momento después en otro momento este mismo parlamento por mayoría absoluta la tramitación se realizó respetando escrupulosamente el ordenamiento jurídico este parlamento

todos los jueves proposiciones no de ley y otras resoluciones este parlamento también aprobó un proyecto del nuevo estatuto tan válida señor basagoiti y respetables son

a partir de aquí he presentado mi planteamiento como lehendakari está recogido en mi discurso de legislatura y en mi programa de gobierno en el programa del gobierno vasco mi planteamiento es y mi deseo sería señor basagoiti constituir una ponencia parlamentaria

todos podamos hablar y acordar todas y todos todo vivimos una oportunidad en el presente que no hemos conocido en el pasado
mi compromiso es aprovechar esta oportunidad para construir un nuevo futuro señor basagoiti eskerrik asko lehendakari jauna

gracias señor lehendakari por su respuesta pero sigue sin concretar una cosa es que diga que habrá una ponencia otra cosa es cuáles son sus verdaderas intenciones

con la respuesta que me ha dado a apuntar alguna cuestión clave en el plan

no vaya a ser que alguien acuerde por mayoría que sobre una parte de la sociedad vasca porque no es nacionalista por lo tanto se podrá acordar lo que está en el límite de la ley

es que los principios del nuevo estatus político para euskadi son muy parecidos

plan ibarretxe un enredo que acabó como acabó permítame que le diga con todo el respeto que ibarretxe se ha colado en su programa en su plan de gobierno

demuestran que faltan lecciones por aprender tropiezan con la misma piedra que les sacó del gobierno insisten en llevar a este país a ese desencuentro

vasca se lo digo con claridad y no le reprocho

la poca responsabilidad de situar otra vez en sus prioridades la ruptura de colocar su plan de gobierno de ponerla en su planteamiento para esta

claro y sin rodeos como a mí me gusta señor urkullu

tipo ibarretxe asuma que la estabilidad que necesita se le escapa por la ventana por lo menos aquella que depende de este partido y que representa al gobierno de españa le pido que no agranden más la incertidumbre en la economía de la crisis con planes que puedan romper ni en el dos mil trece ni en el dos mil catorce

con un plan parecido con palabras edulcoradas antes

todo se puede acordar esperemos que lo que se acuerde sea democrático y respete la ley

esa obsesión por plantear la ruptura la separación con el resto de españa trae incertidumbre y trae desconfianza como está pasando en cataluña con su económica y como pasó en la época del plan ibarretxe con la división social y económica señor

traiga a este parlamento iniciativas gobierne pero no se empeñe en proyectos fracasados no se empeñe en proyectos de división no se empeñe en proyectos de ruptura elija señor urkullu o plan como el de ibarretxe para gobernar elija o plan ibarretxe o progreso de euskadi eskerrik asko

similitudes y diferencias y me plantea ahora en su segunda intervención desencuentros y rupturas mire

y de incumplimientos por ejemplo permítame que hablando de diferencias sabe usted lo que me habría gustado escucharle a usted me habría gustado escucharle defender el cumplimiento íntegro del estatuto de gernika

aprobado por las cortes españolas pero aprobado también por los ciudadanos y ciudadanas vascas

y la asamblea de parlamentarios vascos constituyó una ponencia que dio como resultado el proyecto

han pasado treinta y cinco largos años no formábamos parte de la unión europea

debemos adaptarnos a los nuevos tiempos lo que propongo es que volvamos a constituir una ponencia como hace treinta y cinco años con la diferencia de que esta vez participemos todas y todos

tenemos suficientes razones para abordar esto que usted califica como un problema pero que yo prefiero calificar como una oportunidad y también como una necesidad señor basagoiti

los parecidos razonables o no razonables los vamos a decidir en esta cámara previamente yo he planteado un procedimiento usted podrá plantear sus opciones si entre todos y todas

los meteremos a la aprobación en el parlamento vasco y si lo que sale y no quiero prejuzgar nada

un proyecto de reforma o un nuevo estatuto ese nuevo estatuto

deberá obligatoriamente ser refrendado en última estancia por la sociedad vasca no hay atajos

gracias presidenta buenos días a todos tengo que empezar diciendo que me parece absolutamente inaceptable que esta presidencia haya vuelto a permitir

maneiro jauna denbora aurrera dihoa jarraitu zurean debo decir que quien habla de presos políticos

gracias presidenta señor lehendakari su gobierno ha tenido que retirar su proyecto de presupuestos tras no haber logrado apoyos suficientes para aprobarlos tras una larga travesía de cinco meses

sin liderazgo sin apoyos económicamente inactivo

al negarse permanentemente a negociar y pactar con el resto de grupos parlamentarios durante sus cinco primeros meses de gobierno no ha logrado fraguar

indispensable para poner en marcha las medidas que euskadi necesita y para trasladar la confianza y la certidumbre que los ciudadanos vascos necesitan necesitamos en estos momentos han sido cinco meses perdidos justo en el peor momento de la crisis económica hace diez días

usted hizo un llamamiento expreso al partido socialista de euskadi

para alcanzar un acuerdo de estabilidad a tres bandas excluyó voluntariamente a upyd de ese acuerdo de ese posible acuerdo de estabilidad

en el último turno de su comparecencia solicitada a petición propia para explicar su programa de gobierno y cuando el resto de grupos no tenía ya oportunidad de responderle

de una especie de cumbre de partidos políticos con representación parlamentaria en paralelo a otro encuentro o encuentros con los tres diputados generales y eudel encuentro que efectivamente se produjo anteayer

el propósito del encuentro entre partidos políticos con representación parlamentaria es la puesta en marcha de determinadas medidas económicas

en la que nos encontramos usted habló de la posibilidad de impulsar una reforma fiscal habló de un plan integral de lucha contra el fraude fiscal

del sector público empresarial y de una serie de medidas para la dinamización de la economía y la creación de empleo a través de la aplicación y el impulso de una serie

no se trataron algunos de estos asuntos queríamos preguntarle por qué razón por qué no se trataron algunos de estos asuntos por qué no se habló de reforma fiscal por qué no se habló de plan integral o conjunto de lucha contra el fraude fiscal por qué no se habló o si se habló de la puesta en marcha de un plan para el adelgazamiento de la administración y de su sector público empresarial quería que nos lo explicara porque supuestamente estas reuniones eran para hablar de todos estos temas no solamente de algunos no sabemos si en el futuro podrá hablarse de estos temas queríamos por lo tanto que nos lo explicara teniendo en cuenta los precedentes y en relación a los precedentes me refiero

la incapacidad manifiesta de llegar a acuerdos con nadie sobre nada y teniendo en cuenta además que algunas de estas medidas han sido permanentemente rechazadas por el partido nacionalista vasco y hablo de la reforma fiscal hablo de la puesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal etcétera nos tememos señor lehendakari que estemos

para ganar tiempo y salvar al menos temporalmente las criticas generalizadas sobre su inacción política y la falta de apoyos parlamentarios

un par de fotos que contrarresten su soledad

más que humo esto nos preocupa y nos preocupa mucho es decir que pueda utilizar incluso estas reuniones como digo para ganar tiempo para más allá del verano quizás lograr un acuerdo de estabilidad con el partido socialista de euskadi o no

a día de hoy lógicamente se desconoce estas medidas que ahora se proponen siendo en todo caso insuficientes deberán ser concretadas y explicadas además y más allá de ello el lehendakari debe explicar dónde queda su oferta de pacto de estabilidad y con qué apoyos piensa sacar adelante

de gobierno su calendario legislativo o las medidas que euskadi

le interpelamos sobre las actuaciones que piensa llevar a cabo para impulsar las medidas que euskadi necesita y los apoyos con los que cuenta para poder llevarlas a efecto insisto y qué queda del pacto de estabilidad que usted ofreció hace unos días al partido popular

si esa oferta se mantiene o está ya retirada o si esa oferta se amplía a otros grupos parlamentarios de esta cámara

para hacer durante las próximas semanas o durante los próximos meses cómo ve por lo tanto la estabilidad de su gobierno

para sacar a euskadi de la situación de crisis económica en la que se encuentra y si van

de una vez por todas que el partido nacionalista vasco es un partido como los demás si van a asumir que al estar en minoría están ustedes obligados

es decir están en minoría y por lo tanto ni siquiera basta con dialogar sino que tienen que asumir planteamientos de otros grupos políticos

de esa realidad o todavía no gracias lehendakari

está usted muy mal informado o ha leído mal las informaciones

con los tres diputados generales y la presidenta de eudel en todo caso ya hablaremos de esta cuestión cuando corresponda en todo caso insisto

me la planteó en febrero se la respondí me la planteó en marzo se la respondí

ayer me hizo un planteamiento que acabó siendo el mismo ayer mismo acabo siendo el mismo también le respondí y hoy también le voy a responder señor maneiro solo le pido que quizás podríamos a empezar a ahorrarnos las presentaciones señor maneiro

y lo digo porque fíjese usted todo lo que es capaz de decir como ha dicho en la tribuna también en su interpelación escrita en solo cinco líneas en la presentación de la misma

ha tenido que retirar sus presupuestos por no contar con apoyos lleva una larga travesía de cinco meses en el desierto

económicamente inactivo dando muestras de una inusitada prepotencia se niega permanentemente a negociar y pactar con el resto de grupos todo esto señor maneiro en cinco líneas y todo esto en febrero en marzo en abril y en mayo lo dicho quizás nos podamos empezarahorrar las presentaciones así señor maneiro quizás

en lo que hemos hecho y en lo que vamos hacer zer egin dugu

ya sé señor maneiro que no le parecerá suficiente pero me tendrá que reconocer que

el objetivo es focalizar la imagen de acción inacción soledad debilidad en el lehendakari obviando toda la actuación del conjunto del gobierno y evidentemente de cada departamento pero me tendrá que reconocer que el gobierno no ha estado inactivo me tendrá que reconocer que no nos hemos negado

señor maneiro y desde luego pido disculpas insisto si mi actitud por lo que usted dice ha parecido

sinceramente lo digo con sinceridad insisto porque espero que crea que es así que no ha sido mi intención me pregunta qué medidas voy a impulsar

usted las conoce de primera mano están en este documento que también a usted

las medidas por lo tanto las conoce personalmente conoce usted las medidas para la reforma fiscal conoce usted las medidas para poner en marcha un plan integral de lucha contra el fraude conoce usted señor maneiro las medidas para el redimensionamiento del sector público

en el compromiso de las políticas públicas sí señor maneiro las conoce usted

conoce usted las medidas para la reactivación económica y la creación de empleo usted conoce estas medidas porque se las he explicado personalmente el día cinco de febrero porque se las plantee y le manifesté mi disposición a acordarlas aquí en el parlamento el día quince de marzo

y desde luego señor maneiro volveremos a tratar y contrastar estas medidas en la reunión que mantendremos en los próximos días

este gobierno está presentando y va a seguir presentando las medidas que euskadi necesita lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo hasta la fecha a mi entender sabiéndose que en determinadas circunstancias puede ser que incline la balanza y por lo tanto creyéndose clave usted ha formado parte del grupo del no

del nunca del ninguna si no es como yo digo por mi parte solo le puedo decir que le voy a seguir intentando porque

sí gracias presidenta efectivamente últimamente siempre le digo lo mismo en febrero en marzo

y en mayo solo cambian los meses que lleva en solitario le decía que llevaba dos meses

sin llegar a acuerdos con nadie le decía posteriormente que llevaba tres meses en solitario sin llegar a acuerdos con nadie y últimamente efectivamente lo que le digo y le recuerdo es que lleva cinco meses solo en clara minoría y sin llegar a acuerdos con nadie esta es una realidad o no es una realidad

usted sigue en minoría o no sigue en minoría en fin yo en todo caso no le he preguntado qué ha hecho hasta ahora en todo caso poca cosa

en nuestro ver sino qué va a hacer

y con qué apoyos cuenta esta es prácticamente la pregunta concreta de la interpelación qué es lo que va a hacer a partir de ahora y con qué apoyos cuenta ha explicado aproximadamente qué es lo que usted o a usted le gustaría hacer

seguimos sin saber con qué apoyos puede contar para impulsar

o ese pacto de estabilidad o incluso para iniciar cuanto antes el diálogo y la negociación para que tengamos el próximo año los mejores presupuestos posibles esa es la pregunta del millón la pregunta que se hacen los grupos políticos y la pregunta que se hace un servidor

y ciertamente hay actitudes que no nos gustan la insistencia en llamar boicoteadores a la oposición nos parece claramente injusto al menos por nuestra parte y ustedes lo vienen haciendo nosotros no hemos boicoteado absolutamente nada

por parte de miembros del partido nacionalista vasco nos han dicho que hemos mantenido una actitud

y en las reuniones que hemos mantenido con usted y con el consejero de hacienda no hemos mostrado una actitud boicoteadora sino que lo que presentamos fue una serie de medidas que nosotros pensábamos que tendrían que incluirse en el proyecto de presupuestos

apoyáramos ese proyecto de presupuestos en eso se basa la política creo yo en negociar ustedes tienen que comprender que deberán negociar con el resto de partidos políticos

insistir incluso durante los últimos días por parte de miembros del partido nacionalista vasco en la idea de que todo aquel que no le da la razón a usted o a su gobierno

injusto al menos por nuestra parte porque en ningún caso hemos mostrado esa actitud sino todo lo contrario igual resulta que en euskadi no se está acostumbrado a negociar y a acordar en base a ideas y propuestas concretas igual fue eso lo que ha ustedes les sorprendió que nosotros acudiéramos a la cita con una serie de medidas concretas con nuestros principios esenciales

no hubo ningún tipo de avance en esas reuniones se nos dijo que no nosotros no dijimos que no

a pesar de que entre las condiciones que nosotros planteábamos estaba por ejemplo el plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y la respuesta que se nos dio es que era que en ese momento no que no podía ser pedimos que se nos concretase este plan para el redimensionamiento del sector público se nos dijo que más adelante ya si eso ya se verá y a ver que dicen los demás nosotros lo que hicimos fue plantear propuestas vamos a ver señor lehendakari

no debe pleitesía ni al partido nacionalista vasco ni al gobierno vasco esto no puede ser el partido nacionalista vasco no es el amo del cotarro el partido nacionalista vasco no es el partido único

es el partido nacionalista vasco somos todos por lo tanto tienen ustedes que comprender

que dialogar y acordar con el resto de partidos políticos que es lo que nosotros hemos pretendido hacer

al futuro queremos saber qué opciones ve de cara al futuro para llegar a un pacto de estabilidad y nuevos acuerdos y en todo caso yo le digo

y a las que lógicamente nosotros iremos sin intención de boicotear sino de arrimar el hombro como siempre hemos hecho yo le quiero decir que no necesitamos fotos

porque haya un objetivo de búsqueda de titulares fáciles en los medios de comunicación a determinados recursos me parece que ya está de más pero bueno

va a usted decir lo que es euskadi para el partido nacionalista vasco

el partido nacionalista vasco ha gobernado en la mayoría de las legislaturas con gobiernos de coalición y cómo se consiguen gobiernos de coalición si no es mediante las vías de acuerdo y de negociación me va a usted decir que el partido nacionalista vasco no sabe lo que es euskadi

la vía del acuerdo la vía de la negociación o no será que usted como le he dicho antes se siente clave y está en esa posición del bloqueo nadie del gobierno ha mencionado la de boicoteadores

está basada en una actitud o en una estrategia de sí siempre que sea aquello que yo diga maneiro jauna datozen egunetan

behin egoera hau onartu errazagoa da adostasunetara iristea maneiro jauna señor maneiro hemos tenido por lo tanto ocasión de encontrarnos ya en varias ocasiones

de que tenemos que generar confianza y sin confianza previa es difícil llegar a acuerdos la semana pasada

que ya se ha producido y a continuación convoqué también a los responsables de los partidos políticos y no necesito ninguna fotografía señor maneiro quiero trasladarle

la necesidad de no dejar a nadie al margen ante una nueva oportunidad de acuerdo tras el episodio de la retirada del proyecto de presupuestos que allá cada cual en el caso de que

sean cuales sean las consecuencias señor maneiro con mi convocatoria a todos los partidos quería que todos los responsables institucionales y políticos de este país

convencido de que todavía no hemos llegado a un diagnóstico compartido de la situación que estamos viviendo

no hemos llegado a un diagnóstico compartido sobre la situación del país esta es una responsabilidad que asumo y que voy a seguir trabajando pero es a su vez una responsabilidad sobre la que vamos a tener que responder todas y todos responsables instituciones y responsables políticos quien nos demanda acuerdos y trabajo en común es el país yo así lo percibo

y no vale escudarse en que la sociedad demanda más a unos que a otros o que la responsabilidad es más de unos que de otros no hagamos cálculos señor maneiro busquemos un acercamiento

un mínimo acuerdo de base este pasado miércoles hemos sido capaces de participar de un diagnóstico compartido de la situación institucional porque todos la padecemos

el incremento del paro y nos afecta el incremento de las necesidades sociales y nos afecta el descenso de la recaudación y nos afecta a todas las instituciones esta base de partida común facilita el acuerdo es necesaria

medidas compartidas el diagnóstico común es lo que pretendo propiciar y a partir de ahí los compromisos manifestados compromiso en torno a la reforma fiscal y lucha contra el fraude compromiso en torno al destino de recursos adicionales si los hubiere

compromisos en materias de forma reforma y reestructuración del sector público de la comunidad autónoma y compromisos en relación con actuaciones concretas en su caso en

gracias presidenta señor lehendakari en el debate monográfico sobre empleo celebrado el pasado ocho de marzo se aprobó entre otras

una resolución por la que se reclamaba al gobierno promover diversos planes renove en sectores especialmente afectados por la crisis económica se propuso

en el marco de un conjunto de medidas anticrisis que se aprobaron por mayoría absoluta en este parlamento al comienzo mismo de la pasada legislatura aquello que se llamó

un plan por cierto que su partido denigró con un entusiasmo digno de mejor causa en ese contexto como se recordará el gobierno vasco aprobó diversos planes renove relacionados con la rehabilitación de viviendas renovación de ventanas electrodomésticos muebles comercio

herramienta renovación de calderas y otros sectores de la actividad económica y la experiencia nos ha acreditado que esos planes fueron tremendamente positivos porque tuvieron un efecto movilizador

y por eso mismo contribuyeron también a salvar puestos de trabajo

pensemos por ejemplo que el plan de rehabilitación de viviendas del dos mil nueve con veintidós millónes de euros puestos por el gobierno movilizó trescientos ochenta millónes en inversión

y además incentivo el empleo potenció la actividad de las pequeñas y medianas empresas y aportó ingresos a las arcas públicas

de cerca de cuarenta y ocho millónes de euros o en los resultados del plan renove mobiliario del mismo año

generó una facturación en ventas de ciento sesenta millónes de euros

es decir que por cada euro invertido por el gobierno se generaron otros ocho para la actividad comercial del sector y el dinero que aportó el gobierno se recuperó

que ascendió a los veinticinco coma cinco millónes de euros

que supusieron una facturación inducida de cincuenta y siete millónes de facturación

de más de nueve millónes y datos parecidos se podrían aportar

y del éxito que cosecharon que es público y notorio

a convertirse en su más ferviente defensor iniciativa parlamentaria incluida por cierto esas cosas señor lehendakari hacía aquel gobierno de patxi lópez que según usted no tenía programa y queremos que la siga haciendo su gobierno

que en ese sentido les dejamos y por eso porque sabemos que ese tipo de medidas son útiles y así lo entendemos para la reactivación económica

una resolución sobre promoción de planes renove en el pleno sobre medidas de crecimiento económico y lucha contra el paro han pasado dos meses desde entonces y aún no tenemos la más mínima noticia sobre los planes de su gobierno a este respecto

y no sabemos a fecha de hoy cómo lo va a cumplir o si quiere cumplirlo o si piensa que las resoluciones de un pleno del parlamento que tienen que ver con la vida de la gente son poco más que un adorno floral

no sabemos tampoco si piensa que cumplir un mandato parlamentario

y prefiere reservar esa cuestión para otro tipo de contactos paralelos a lo mejor se los plantea usted al señor patxi lópez en la próxima cumbre que tengan o a lo mejor a decidido esperar

la verdad es que no sabemos nada al respecto porque ni usted ni su gobierno nos dice nada ni parece que han tomado hasta la fecha decisión alguna

desde aquel pleno han transcurrido dos meses es decir poco más o menos ocho consejos de gobierno por medio y en ninguno de ellos se ha tomado decisión alguna sobre la puesta en marcha de los planes renove no sabemos si es porque no saben cómo hacerlo y están esperando a que alguien les asesore

o porque sigue estancado en esas políticas de rigor económico que más que rigor económico supone el rigor mortis de la economía vasca lo cierto es que llevamos

definir las actuaciones estratégicas en este caso además con un mandato parlamentario que definen el curso de la economía en el próximo futuro y como hasta la fecha

para saber cuál es el propósito del gobierno vasco en relación con ese mandato parlamentario del ocho de marzo de implementar planes de ayuda en sectores estratégicos en aplicación de lo que esta cámara

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi señor pastor creo que el respeto al parlamento

de toda duda y ello no es óbice para que otros encuentros que puedan ser provechosos para este país también fueran valorados por todos de igual manera

el lunes dieciocho de marzo de este año el gobierno vasco a través del lehendakari de iñigo urkullu

y de este consejero que les habla presentó el plan para la reactivación del empleo dos mil trece dos mil dieciséis

mil catorce millónes de euros de origen público y privado en el año dos mil trece para generar

y personas que se encuentran con dificultades de acceso al mercado laboral

aporta inicialmente a este plan de reactivación del empleo en el año dos mil trece en principio la cifra de doscientos ochenta y uno millónes de euros el impacto medido en empleo para el periodo global del plan es de cuarenta y cuatro mil nuevos puestos de trabajo y mantenimiento

actualmente existentes dentro de los diversos programas operativos de ese plan

se encuentra efectivamente el programa renove rehabilitación

incentivar la creación de empleo en el subsector de la rehabilitación de edificios focalizando

las políticas de rehabilitación en la mejora de las condiciones de accesibilidad y de eficiencia energética de las viviendas y edificios existentes en euskadi

por su alta intensidad en mano de obra tanto directa como indirecta

actuar sobre el sector de la construcción de euskadi como también lo hizo el gobierno anterior si no hay porqué dejar de compartir aquello que es bueno se estima que

desde el inicio de la crisis está provocado precisamente por este retroceso de actividad en el sector de la construcción y por tanto es necesario incidir sobre el

la situación del sector de la construcción con un alto nivel de desempleo

en euskadi donde el cincuenta y tres por ciento de los edificios residenciales tienen una antigüedad superior a los cincuenta años de los cuales el quince por ciento necesita urgentemente una intervención

o a su deficiente comportamiento energético más del setenta por ciento de las viviendas de este país carecen de la accesibilidad necesaria

un veintinueve por ciento de las viviendas carece de ascensor y un setenta y dos por ciento del parque de vivienda fueron construidos antes del año mil novecientos ochenta

con el aislamiento térmico de los edificios por lo tanto hay una labor que realizar hoy en día existe un amplísimo consenso social yo diría que también político en el que la rehabilitación

tienen un relevante papel el de facilitar la reconversión del sector

por el de poner en valor el parque que ya se encuentra edificado generando para ello un importante compromiso de inversión privada y también de generación intensiva de empleo

calculan una creación de entre ocho y catorce empleos directos por cada millón de euros invertidos en rehabilitación mientras que genera a su alrededor una importante creación

indirecto e inducido facilitando la reconversión como decíamos antes del sector de la construcción la rehabilitación por su demanda de empleo de proximidad tiene además una gran importancia en lo local en las microempresas

de carácter local y mantiene unos niveles altos en el efecto multiplicador de incentivación

en concreto el plan de reactivación para el empleo dos mil trece dos mil dieciséis a través del programa renove rehabilitación busca dinamizar el nicho de mercado de la rehabilitación de edificios dotándolo de un presupuesto inicial de más de cincuenta y cinco millónes de euros a través de tres subprogramas

incentivando a través de ayudas públicas la demanda de rehabilitación vinculada a actuaciones que mejoren la accesibilidad y la eficiencia energética de viviendas

en segundo lugar el renove educación interviniendo directamente en los centros públicos educativos y el tercero el renove salud interviniendo directamente en los centros y equipamientos públicos de salud treinta y cinco millónes en el caso de los educativos y cinco en el caso de los renove salud

se integran y concentran todas las líneas de actividad del programa de vivienda dirigidas a incentivar y apoyar la accesibilidad

y la rehabilitación de viviendas y edificios que se instrumentan en convocatoria de ayudas a la accesibilidad prevista en julio de dos mil trece y dotada inicialmente con un millón ochocientos mil euros

y por la que se pretenden apoyar más de cien actuaciones en planes y proyectos de accesibilidad convocatoria de ayudas para regeneración y renovación urbana de barrios prevista para julio de dos mil trece y dotada con seis millónes trescientos treinta mil euros subvenciones a rehabilitación de viviendas y edificios

dotadas con trece millónes de euros en créditos de pago y once millónes de euros en créditos de compromiso

y constructiva del edificio la adecuación de las condiciones de habitabilidad las operaciones de adecuación de las viviendas y sus accesos a la normativa vigente

actividades de adecuación del acabado general de la edificación de las viviendas a los principios de la buena construcción a estas tipologías tradicionales hay que añadir desde el dos mil once

y la elaboración de los informes técnicos derivados de la inspección periódica de construcciones y edificaciones que vamos a mantener señor pastor se pretende rehabilitar catorce mil trescientos trece viviendas en dos mil trece y sesenta y tres mil viviendas para el conjunto del año dos mil trece al dos mil dieciséis generando

de doscientos cuarenta millónes de euros para este ejercicio del dos mil trece a través de ese efecto multiplicador que también usted ha referido ensu intervención

el conjunto de dotaciones presupuestarias iniciales del programa renove rehabilitación en el área de vivienda implica la movilización de catorce millónes

en créditos de pago dos mil trece y veinte millónes de euros en créditos de compromiso lo que implica una capacidad de gasto inicial global de más de treinta y cuatro millónes de euros

de estos planes renove a través del ente vasco de energía también se va a continuar con algunas de las líneas de subvención que usted también

para la mejora del ahorro y de la eficiencia energética habrá un plan renove para la modificación de ventanas dotado de uno coma tres millónes de euros

de un plan renove en el área de electrodomésticos dotado también con otros uno coma tres millónes de euros y también un programa

para la renovación de calderas dotado con cero coma cuatro millónes de euros

le agradezco la información señor aburto aunque esperaba la contestación del lehendakari

y puede ser importante en el sector de construcción y de vivienda los planes renove del resto que ustedes anuncian no parece que tengamos conocimiento alguno por ningún acuerdo de los consejos de gobierno en cualquier caso me parece loable y es la línea que nosotros aprobamos en aquel pleno monográfico

que sinceramente considerar las obras de rehabilitación mejoría y acondicionamiento en edificios públicos educativos o sanitarios

que aquello que ya existía como actuaciones en el departamento de sanidad y de educación que tenían ese mismo objetivo les cambiásemos el nombre y pasásemos a llamar lo que eran obras de rehabilitación de mejora de inversión e infraestructura se pasen a llamar planes renove y así vestimos mejor el muñeco

encima de la mesa en cualquier caso las decisiones del parlamento y su puesta en marcha se ponen en marcha por acuerdos de gobierno y ahí no necesitan ustedes compromisos

se trata de que decidan de que tomen decisiones de que pongan en marcha medidas que estas sí son competencia del gobierno sin necesidad de mayores acuerdo y sin escusas para dilatar la toma

que determinados supuestos planes que se llevan a cumbres mediáticamente muy potentes pero que se acaban convirtiendo como la última en una especie de cumbres borrascosas

es verdad o no lo es no puedo poner yo mi decisión en ninguna de las dos porque no estuvimos presentes pero no parece que ese tipo de actuaciones creo que poco y mal preparadas sean la solución para los problemas del país

que de la misma forma que puedo dar el visto bueno del partido socialista a ese plan renove en materia de vivienda y construcción sería necesario adoptar también medidas

a los que me alegro que ustedes hayan acabado conviniendo en que efectivamente eran

los que el gobierno anterior puso en marcha a pesar desde que la bancada del pnv se dijeron bastantes barbaridades sobre la eficacia y la puesta en marcha de dichos planes las reconversiones están bien y las rectificaciones mucho mejor

por ello porque reconocieron que quizás los socialistas no hacían las cosas tan mal

en aquellos momentos eskerrik asko pastor jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak

señor pastor yo creo que este gobierno decididamente va a mirar hacia adelante no queremos hablar

ni tampoco de la mala herencia no queremos hablar de la herencia esta sociedad tiene demasiados retos como para que unos y otros sigamos siendo esclavos de un reciente pasado yo creo que es hora de mirar hacia adelante

empeño está este gobierno y está en ese empeño y convoca aquellas cumbres como usted ha calificado que considera importantes precisamente para responder a esos retos de país o no es importante

doscientos cuarenta y cinco millónes de euros para un plan para la reactivación económica para otro plan

eso no es importante señor pastor aunque ustedes no hayan estado en esa reunión

próximamente y de compartir con el lehendakari esos retos de país y las soluciones a los mismos solamente entre todos podremos sacar adelante los retos que tiene este país no tenemos

ninguna duda el esfuerzo inicial

de reactivación del empleo que les he comentado va a ser objeto de un importante refuerzo precisamente porque consideramos de común acuerdo diría yo que ese plan renove en el ámbito de la construcción es importante aunque pueda haber otros pero ese plan es importante

y por ese amplio peso que tiene en la actual crisis que estamos viviendo

con las diputaciones forales y con eudel el margen de holgura presupuestaria que va a implicar el relajamiento del déficit si es que finalmente se produce

y por lo tanto en recursos adicionales en el caso que nos afecta del plan renove de rehabilitación de vivienda las citadas instituciones públicas han acordado activar un fondo como decía de solidaridad para el empleo dotado de cuarenta millónes

haya o no haya relajación del déficit hay un compromiso del lehendakari de dotar internamente si no fuera posible de otra manera al citado plan con un fondo extraordinario decía de cuarenta millónes de euros y uno de los destinos de ese fondo va a ser el reforzamiento del plan renove el refuerzo del mismo con diez millónes euros adicionales que va a tener una incidencia

directa en el empleo tanto directo como indirecto con independencia de las cifras finales que resulten una vez establecida esa cifra

y que consiste en el elevado ritmo de ejecución de las políticas de rehabilitación que estamos comprobando desde el departamento de empleo y políticas sociales en el área de vivienda y su salto cualitativo al contemplar ya con rotundidad y efectos económicos destacados actuaciones de eficiencia energética envolvente de los edificios este refuerzo presupuestario del plan renove vivienda consolida a nuestro modo de ver las bases de la reestructuración de la actividad

el sector vasco de la construcción precisa acometer con urgencia este es nuestro compromiso ante el parlamento y espero que sea compartido señor pastor

gracias señora persidenta luego se leerá una declaración institucional pero hoy

hace cuarenta años el nacimiento de frente polisario desde luego nuestra solidaridad

hay presos políticos pero en españa no vaya por delante señor lehendakari en un reciente comunicado

para la democracia ha considerado que el instituto vasco de consumo kontsumobide ya no es imparcial para resolver sobre el asunto de las aportaciones subordinadas de fagor y eroski

del instituto los jueces de la asociación mencionada han llegado a esa conclusión

al entender que defiende la actuación de eroski fagor y caja laboral al comercializar además y eso es importante también los afectados

y además están ciertamente disgustados y lo han planteado así recientemente yo le hago esa pregunta a usted señor lehendakari porque usted también

hizo declaraciones en el sentido de trasladar a kontsumobide la mediación

y en ese sentido usted se ha mojado también en esta cuestión así como su grupo parlamentario y otros grupos parlamentarios

en relación con esta cuestión que tiene cierta gravedad y cierta repercusión efectivamente una asociación de jueces ha valorado un

nosotros queremos preguntarle señor lehendakari cómo valora usted las declaraciones realizadas por la asociación de magistrados jueces para la democracia al considerar que kontsumobide

ha perdido imparcialidad en el asunto de las aportaciones subordinadas

en una entrevista periodística que todos hemos podido leer muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jaunak dauka hitza

lehendakari jauna señor barrio este gobierno no considera oportuno valorar las declaraciones de la asociación profesional

no tenemos por costumbre entrar en este tipo de valoraciones además de hacerlo nos parece que no aportaría nada a la solución de un problema

para todas las partes implicadas lo que estoy seguro compartiré con su señoría eskerrik asko darpón jauna

habló de este tema yo sé que lo razonable en función de la materia

usted no tengo ningún inconveniente lo cierto es que en este tema se ha creado una situación una situación

de jueces se mete en materia en un comunicado para denunciar una situación de falta de imparcialidad de un órgano de la administración no judicial es ciertamente inusitada esa situación o sea que

gravedad en el comportamiento de la dirección de kontsumobide y es una situación complicada

es complicada todos hemos leído la entrevista de la señora greaves y tienen

los afectados dejan de creer en el papel de kontsumobide el parlamento y algún grupo parlamentario además se mete también en esa complicación donde dije digo digo diego esta situación la ha complicado a algún grupo parlamentario que ha rectificado de una manera importante estamos en una situación de exigir

y responsabilidad señor consejero la directora parece que ha funcionado como bombero pirómano y nosotros no vamos a ser maximalistas en relación

y le exigimos a usted una reflexión en ese comportamiento ha dicho que no quiere valorar

porque ha habido un error porque ha habido un fallo y el gobierno absolutamente tiene que rectificar por responsabilidad tiene que reflexionar
o tiene que darnos una explicación seria y no evadirse muchas gracias eskerrik asko barrio jauna jarraian

pero permítame que no valore las declaraciones de una asociación profesional que además no nos los ha mandado directamente hace dos meses

de la situación así como el planteamiento de posibles soluciones este es el camino que en nuestra opinión se debe seguir a pesar de que su interés por el asunto es legítimo

pensamos que las valoraciones ahora mismo no aportan nada a la solución solución que deseamos

en las partes implicadas y en facilitar el acuerdo que satisfaga las mismas dejemos trabajar a los profesionales de kontsumobide que lo harán con compromiso e imparcialidad entre las partes

es del señor jon azua ex vicelehendakari pero creo que capta la perfección el espíritu del mensaje

las personas también en economía no solamente importan sino que son imprescindibles eskerrik asko darpón jauna

pero no quiero darla por reproducida sin explicar los motivos el veintidós de marzo del dos mil doce en

se presentó aquí una moción en la que planteaba la exigencia de que el gobierno llevará a cabo

como consecuencia de que la ley tres barra dos mil once de creación de lanbide planteaba en su disposición transitoria un plazo de cuatro meses que ya había sido superado

no votó esa moción y mayoritariamente por cincuenta votos dos tercios de la cámara salió adelante esa pretensión esa urgencia de que se hiciera en dos meses la relación de puestos de trabajo en lanbide la pregunta visto el interés de la cámara la presenté

sin embargo como usted bien sabe en el orden del día de las preguntas a realizar intervienen los portavoces y el nuestro el portavoz del grupo socialista en un gesto que le honra ha demorado la presentación de la pregunta en el orden del día al objeto de que trascurrido el tiempo haya todas las posibilidades de que la respuesta

sea positiva por lo tanto termino diciendo la pregunta en los términos en los que está está el señor consejero en disposición de comprometerse a realizar dicha relación de puestos de trabajo
en el plazo de dos meses eskerrik asko itxaso jauna

cuando consigna en el escrito por el que formula la pregunta el hecho de que lanbide

el actual de dramática presencia del paro y de urgente intervención de los poderes públicos en la

de que durante la pasada legislatura se debatió ampliamente sobre este particular y en concreto

se debatió intensamente en cualquier caso estoy seguro de que no se le oculta a usted cuál es la dificultad

de una plantilla que constituye sin exagerar un auténtico mosaico multicolor con

entre los que conviven dentro de lanbide hay funcionarios

y entre las procedencias existen desde los calderos hasta los procedentes de la dirección de empleo y los contratados por la propia lanbide prácticamente muchos de ellos

de ente público derecho privado durante los últimos meses

y la viceconsejera de función pública están trabajando intensamente en la ordenación de este

para cuándo estará lista mire la respuesta está hecha por diferentes portavoces del gobierno en la comparecencia que tuvo lugar en la comisión correspondiente el seis de febrero por parte del consejero de empleo dijo muy cautamente que desde luego antes de fin de año él decía que era muy cauta esta misma semana el miércoles el ocho de mayo el viceconsejero de función pública comparecía en la comisión correspondiente y decía que

antes del treinta y uno de octubre por tanto como este gobierno está coordinado

y probablemente antes del treinta y uno de octubre muchas gracias eskerrik asko erkoreka jauna itxaso jauna zurea da hitza

pero permítame decirle que yo en ningún caso pude negar la virtualidad de hacer una relación de puestos de trabajo porque es una disposición normativa de una ley emanada de este parlamento en todo caso si ha visto esos vídeos verá que lo que planteaba mi grupo

la dificultad que hacía imposible que se pudieran cumplir ese plazo perentorio

y le agradezco tanto la franqueza que no voy a hacer sangre con las cosas que hubo que oír aquí sobre la exigencia de hacerlo en ese plazo y en ese tiempo tan breve sin embargo creo que sería

fue una proposición de ley que sacaron entonces los grupos de oposición sobre la técnica legislativa y sobre

sobre el hecho de que tendrán que adecuarse mejor a la naturaleza de los hechos y a las probabilidades

con las cosas que se dijeron pero convendrá usted conmigo señor erkoreka

en la vida como en la política no son fuente de inspiración para la confianza nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna eta amaitzeko erkoreka jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea efectivamente he sido franco y voy a seguir siéndolo cuando

me pregunté qué pretende hacer un planteamiento constructivo o viene a sacarse la espina de la pasada legislatura afortunadamente veo que es lo primero y por tanto me congratulo por ello me tendrá a su disposición y supongo que el consejero de empleo exactamente igual para informarle puntualmente de la marcha que llevan los trabajos de elaboración de la rpt esta misma semana en el consejo de gobierno

una medida importante en relación con el personal de lanbide de cara a su progresiva normalización se aprobaron unas medidas de cara

de apoyo a la implantación del nuevo modelo de gestión y tramitación del rgi un plan del que se ocuparán funcionarios interinos

que es una figura específicamente contemplada en el estatuto básico del empleo público

para este tipo de programas es una medida que hemos tomado esta misma semana de la que supongo que tendrá conocimiento porque está en todos los documentos relativos al consejo de gobierno pero no tengo ningún inconveniente en informarle sobre este y sobre otros acuerdos que van a sobre el particular congratulándome por el hecho de que efectivamente la venalidad

langileentzako pregunta cuál es la repercusión económica estimada de la supresión de parte del personal eventual e interino respuesta

josu iñaki erkoreka gervasio de dónde salen estos diez millónes trescientos

de contratos que no se van a prorrogar de trabajadores y trabajadoras interinas del sector público de sustituciones que no se van a hacer en el sector público si no de dónde salen estos diez millónes trescientos once mil euros

invertir en empleo público no es crear privilegios

me habla de la seguridad jurídica y tiene teorías parece ser que muy elaboradas al respecto usted es jurista ya lo puedo comprobar

estudiaría la teoría general de la norma jurídica y la relación de normas jurídicas en el tiempo

de igual o de inferior rango en todo lo que sea incompatible y la norma también que decía que la derogación de una norma no restablece vigencia de las que aquella hubiese derogado verdad la derogación de ese decreto que es lo que pide la resolución

sin hacer ningún planteamiento alternativo que supongo que es imposible entre otros entre upyd

y eh bildu salvo que me demuestran lo contrario qué es lo que generaría aquí

porque las normas anteriores de igual o inferior rango al decreto que ustedes pretenden derogar ya están derogadas por el decreto en todo lo que sean

con el enganche de las normas básicas del estado en vigor ese real decreto ley

de eh bildu cumplió a rajatabla desde el primer día como el de ondarroa y como el de otros muchas gobernados por eh bildu usted critica aquí lo que ustedes hacen

me habla de la inseguridad jurídica inseguridad jurídica es la que se generó en este país

cuando el ejecutivo anterior estuvo durante todo el segundo semestre asegurando que iba a haber paga extra

hicieron todos previsiones de que efectivamente contaban en navidad con la paga extra y después el tribunal constitucional se lo arrebató esto es inseguridad jurídica es jugar

por una pose política una cosa y luego resulta la contraria mire no es lo mismo no contratar que es lo que puede ocurrir en osakidetza como consecuencia de la ampliación

con algún o parte del personal eventual que está cubriendo turnos ahora bien despedir es otra cosa eso sí que es destruir empleo público y despedir es por ejemplo lo que ha hecho el alcalde de bildu aplicando la reforma laboral de rajoy sobre la capacidad de creación de empleo público de eh bildu en las administraciones que gobierna tengo aquí unas cifras que no tengo tiempo para explicárselas

en gipuzkoa fíjense la reducción de la creación del empleo público en la administración local y foral desde el año dos mil once que entran ustedes a gobernar es espectacular cincuenta y ocho puestos de trabajo nuevos se crean en dos mil doce de ciento treinta y ocho que había el año pasado cuando entraron ustedes a gobernar y este año llevamos dieciocho o sea la destrucción de empleo es fatal eso de crear empleo público que hagan los demás y nosotros donde gobernamos nada

ni siquiera es fruto de la acción de las fuerzas de la naturaleza

como la de lo que nos está cayendo o con la que nos está cayendo porque eso que nos está cayendo tiene responsabilidades y esas responsabilidades como decía no son sino imputables a la acción de otras personas

de gobiernos tutelados y sumisos al poder y la preeminencia de los beneficios empresariales por encima de los derechos de los y las trabajadoras

que en su génesis en su origen lleva marcada la desigualdad como factor de arranque de todo el proceso es en resumen el capitalismo y las medidas que de él emanan desde nuestro punto de vista

existen también víctimas multitud de víctimas tantas

somos mayoría los que sufrimos las medidas de recortes ajustes austeridad y pérdida de derechos sociales y laborales en este país para no irnos más lejos no menos de doscientos treinta y siete mil mujeres y hombres en paro

en la acción en la política de sus administraciones de sus gobiernos un asidero al que agarrarse para no naufragar en el abismo de la exclusión social al que ya se han precipitado decenas de miles de personas en esta comunidad y en el conjunto del país

y sí en la pancarta como usted señalaba hoy en una entrevista radiofónica en la pancarta cuantas veces haga falta lo que no entendemos es por qué

han utilizado la pancarta quizás para otros motivos pero sin ningún tipo de temor pero no solo en la pancarta incluso con paraguas si hiciera falta para animar

de respuesta o de reprobación sea ante un palacio de justicia o sea ante una delegación de gobierno familien eroste ahalmena

eso sin hablar del desempleo juvenil donde los porcentajes por desgracia son todavía mayores o

a las mujeres que son las que ocupan en su mayor parte algunos de los puestos de trabajo que están siendo más castigados con las sucesivas reformas del gobierno de rajoy como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la ley de atención a cuidados y a la dependencia de las personas

ajustes a la apropiación indebida a la sustracción o al robo porque eso es lo que es de parte de los salarios de los funcionarios públicos a la vez se amparan los minijobs esa fórmula para insertar a los jóvenes al mercado laboral en condiciones

a la congelación de las pensiones al aumento de la edad de jubilación y a intromisiones intolerables no solo de palabra sino probablemente nos gustaría que fuera también de echo intromisiones intolerables

no sé a usted señor consejero pero a mi grupo se le antojan razones más que suficientes para no quedarse quietos para moverse

convocada para este treinta de mayo en hego euskal herria y ya sé que en esta misma cámara también ayer escuchamos que no era el momento de hacer huelga que tocaba trabajar pero si eso es lo que quiere la ciudadanía trabajar a quién le toca trabajar al que puede

luchar para conseguir un puesto de trabajo y sí en la pancarta y donde haga falta

su desempleo se va a convertir en un tránsito hacia la desesperanza sin remedio

cuarenta y cuatro y ninguna de ellas ha logrado los objetivos con las que fueron anunciadas como benefactoras para un escenario mejor para el conjunto de la sociedad a saber

más bien ha sido todo lo contrario y creo que en eso podríamos estar de acuerdo también porque cada una de ellas cada una de esas reformas laborales ha sido una voladura controlada y sistemática del modelo de protección social y los derechos laborales y sociales de sus destinatarios la clase trabajadora y la última de ellas

porque esta reforma acaba como digo con los pocos mecanismos que aún tenían los y las trabajadoras

porque hay quien agrede y hay quien es agredido sistemáticamente

condenando en una fecha mítica hasta ahora por motivos alegres y festivos como el siete de julio a partir de ahora también el gobierno de rajoy pretende amargarnos la fiesta

a partir del siete de julio a más de trescientos cuarenta y tres mil trabajadores y trabajadoras al abismo que supone ver mermados su salario

en la medida en que expira el plazo instaurado por la reforma para la

una reforma que invalida y despoja de valor a la negociación colectiva desplazando los ámbitos hacia el estado a través de mecanismos como la comisión consultiva nacional de convenios colectivos

de cualquier peso o capacidad de revertir todo lo que la patronal desee hacer y no se trata de que yo dibuje a la patronal de manera perversa intuya lo que creo o me gustaría que hicieran

pero renunciar a la legislación vigente es decir a la reforma laboral sería una irresponsabilidad no nos cabe ninguna duda de que no van a ser desde su óptica irresponsables con esto

promueve leyes y reformas que los persiguen todo un ejemplo del fervor antropófago que anima a los seguidores del capital en el estado español y en europa y por si fuera poco

la capacidad de romper los acuerdos o convenios pactados a su antojo vía descuelgue un descuelgue que solo necesita justificarse en la continuidad de seis meses

una reducción de plantilla o para luego justificar cualquier tipo de medida que ataca directamente a los intereses de los y las trabajadoras pero no es solo eso también quieren imponer el arbitraje obligatorio sabiendo como saben

y en algunos casos directamente servil de muchos gobernantes

a los elementos de protección que guardaba el derecho laboral para lo que consideraba la parte más débil de la relación laboral y eso también es ley pero eso también se va a incumplir porque aquí no hay garantías para la parte más débil de la relación laboral

guante de seda para los poderosos puño de hierro para los más débiles para la clase trabajadora

le interrogamos sobre qué piensa hacer qué piensa poner en marcha y hablamos en un tiempo verbal futuro porque hasta la fecha no hemos podido ver nada de aquello que

que oteamos daría respuesta a lo que esta cámara sancionó

y cito o leo como ejemplo algunos de los acuerdos de ese monográfico

que soporta en su acción de gobierno junto con el nuestro el partido socialista y upyd

y precarizar las relaciones laborales individuales y colectivas el parlamento vasco insta al gobierno de españa a promover la derogación de la reforma laboral podría seguir citando otro

acuerdos estos sí son acuerdos ahora lo que hace falta es que se cumplan esos acuerdos u otra

en la consolidación de un marco vasco de relaciones laborales un sistema vasco de relaciones laborales

onak lortzea no voy a discutir o contrastar modelos económicos

pero lo cierto es que compartimos modelo económico y también modelo social con los países del mundo con mayor nivel de desarrollo humano

de logros y avances en materias sociales y laborales países

a la crisis se nos pregunta por qué medidas concretas tomará el gobierno para promover el ámbito

apoyado en la mayoría de este parlamento como decía en euskera dos vías hay para lograrlo la competencial y la vía de los hechos entendida esta no como el incumplimiento del marco legal sino mediante la negociación de acuerdos de aplicación en euskadi entre los agentes competentes en la materia

el artículo doce del estatuto de autonomía del país vasco dice que corresponde a nuestra comunidad autónoma la ejecución de la legislación del estado en las materias siguientes legislación laboral asumiendo las facultades y competencias que en este terreno ostenta actualmente el estado respecto a las relaciones laborales procurando que las condiciones de trabajo se adecuen al nivel de desarrollo y progreso social promoviendo la cualificación de los trabajadores y su formación integral nos corresponde por tanto la ejecución nos gustaría

las condiciones de trabajo de los ciudadanos y ciudadanas vascas pero en este momento nos guste o no y no nos gusta estamos sujetos a la legislación básica del estado esta realidad sin embargo no impide el hecho de que sigamos reclamando mayores cotas de autonomía

así como manifestarnos en contra de las reformas laborales impuestas en todos aquellos foros donde tenemos la posibilidad de hacerlo

si tenemos posibilidades de actuación por la vía del acuerdo de quienes son los actores principales en esta materia en euskadi además del propio gobierno vasco los sindicatos y las patronales

en las legislaturas en las que el pnv ha tenido responsabilidad de gobierno responsabilidades compartidas en muchos casos con diversos partidos políticos se ha conseguido por la vía diálogo la negociación y el acuerdo los siguientes logros

creación del consejo de relaciones laborales en materia de empleo planes propios de empleo desde la falta de competencia pero acogiéndonos a la competencia de fomento mucho antes de la transferencia de las políticas activas de empleo en materia de formación hobetuz

ya que han marcado la cuestión en la situación de crisis la creación en su día

fuimos la primera comunidad del estado que pusimos en marcha una renta de este tipo

está bien recordarlo de vez en cuando renta que está dando cobertura a miles

renta que está siendo soporte de la cohesión social miles de trabajadores y trabajadoras que se mantienen gracias a ella una vez agotada las prestaciones previstas por el gobierno del estado

sintámonos reconocidos en una renta que está dando soporte a la cohesión social se podrá mejorar

pero reconozcámoslo que existe la creación del consejo de las relaciones laborales fue precisamente una forma de promover el marco vasco de relaciones laborales

eso sí en aquel momento entre empresarios y trabajadores con capacidad de acuerdos que pueden incidir en las condiciones de trabajo y digo en aquel momento porque no voy a valorar cuál es la actitud que está desarrollando cada uno de los agentes

de debate y de acuerdo posturas legítimas evidentemente

ni entendemos ni compartimos posturas de no participación en los foros que hemos constituido

no nos sirven excusas de todo tipo para justificar la inasistencia a unos foros en los que se tiene la oportunidad de manifestar todas las posturas y contrastarlas y debatirlas con el resto de los agentes sociales nosotros respetamos absolutamente el principio de autonomía de las partes como no podía ser de otra manera

de necesidad de trabajo en común son tiempos para la cooperación no tiempos para la confrontación desde el inicio de la presente legislatura

la prioridad de este consejero ha sido y está siendo potenciar y posibilitar el diálogo entre las partes

de gasolineras del convenio gasolineras podría referirme al acuerdo de cementos lemona y a tantos otros

en varias ocasiones es pronto para saber qué frutos

lo sabremos pronto porque el tiempo apremia pero si no se llega a algún consenso no será en todo caso por no haberlo intentado de manera intensa en estos pocos meses de legislatura hemos mantenido hasta cinco rondas de reuniones bilaterales con todas

para conocer sus posiciones y actuar en consecuencia

un suelo común que facilite un acuerdo un acuerdo en beneficio de los trabajadores y trabajadoras de este país conocidas las posturas de cada una de ellas iniciamos el camino para fomentar un foro de encuentro el que fuera porque nos apremia el contenido y no la forma llámese mesa social o llámese de otra forma un foro de encuentro donde se pueda practicar

para facilitarlo hemos hecho algo más que intermediar hemos facilitado reflexiones y documentos técnicos elaborados por personas expertas en la materia

de las organizaciones más representativas nosotros esperamos que el trabajo de este grupo unido a la intermediación del gobierno vasco y a la disposición de los agentes sociales posibilite un acuerdo interprofesional en euskadi

que la próxima semana culminaremos otra nueva ronda de conversaciones en búsqueda de ese acuerdo que consideramos fundamental y que creemos posible

un acuerdo propio de aplicación en nuestro territorio y que dé una mayor cobertura a la negociación colectiva porque la reforma laboral ha introducido un modelo que rompe el que existía

yo también comparto con usted señor matute que la reforma rompe el modelo

que nadie se equivoque y que no quede por reiterar nuestra postura una y mil veces a nosotros

estamos en contra de la reforma laboral no nos gusta por tanto la forma en la que se aborda la misma como por la nula capacidad de defender nuestro propio marco de relaciones laborales

a la que somete a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras vascas

que el contexto que hemos descrito le parezca una indefinición ideológica que no aterriza en el tema yo he intentado exponer cómo está la situación es dura yo entiendo y además creo que seguramente compartimos que es difícil no

de la regulación únicamente de leyes de la idoneidad o la razonabilidad de unas u otras leyes estamos hablando de criterios y de impulsos políticos de un modelo político o de otro modelo político nosotros decíamos que no es momento de parches que no es momento de cesiones

y no creemos que el papel de un gobierno sea el de situarse en medio el de buscar arbitrajes el de buscar equilibrios porque no puede haber equilibrio

es agredida sistemáticamente cuando el empresariado está buscando leyes y favoreciendo la creación de leyes que fortalecen sus posiciones en detrimento de la mayoría de la ciudadanía que seguramente usted señora aburto igual que yo coincidirá en que es la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas vascas hay que tomar partido como decía gabriel celaya tomar partido hasta mancharse porque lo que no puede ser

de árbitro una actitud de ecuanimidad lo que se está haciendo es favorecer una agresión sistemática a los derechos de la clase trabajadora y eso es lo que está pasando yo no le voy a culpar a usted de que eso esté sucediendo

más allá de la proclamación de su rechazo a la reforma laboral para que no siga produciéndose

de empezar a transicionar hacia otros modelos económicos políticos y sociales y ahí es donde tendría que estar la cuestión del debate acuerdos para qué porque usted ha señalado la existencia del imi y está bien recordarlo y a mí no me duelen prendas seguramente a mi grupo tampoco en reconocer que eso supone un avance con respecto a la nada

que eso fue una devaluación de una carta de derechos sociales que entró a este parlamento con contenidos muchos más elevados

que hubiera permitido probablemente que ese imi no fuera visto en ningún caso

y usted habla de posturas legítimas no todas las posturas son legítimas no es legítimo amparar y defender

parte de la sociedad a una pequeña parte de la sociedad que acapara la mayoría de los recursos de esta sociedad y además arremete contra la mayoría de la ciudadanía no es legítimo a usted

no le han elegido para que determine en modo equilibrio en una posición de ecuanimidad qué le parecen las cosas sino para que hagamos cosas para cambiarlas

y no nos vale como le decía el recurso a la obligatoriedad de cumplir la ley porque las leyes

de fuerzas sindicales sociales y políticas son por tanto la traducción de una determinada voluntad o impulso políticos

menos justas y se pueden hacer cosas diferentes se puede optar por defender a los trabajadores en un conflicto

con todas las trabajadoras no dándole la razón a adegi no buscando paños calientes con adegi o se puede por el contrario esa ecuanimidad que parece justa pero no lo es porque además son ellos la patronal

que ellos mismos se brindan para sí son ellos los que incumplen con las horas extras no remuneradas

esos son incumplimientos de leyes que ellos hacen y sin embargo nosotros planteamos no seguir

como le decía podemos hacer cosas diferentes y le invitamos a que lo haga y le décimos más si lo hace eh bildu le va a apoyar porque aquí no se trata ahora de que nos lancemos como se suele hacer por parte del vicelehendakari o del portavoz del gobierno vasco sobre qué instituciones se hacen o no se hacen aquí existe aunque en precario

bai eskerrik asko mahaiburu andrea se nos dice que

no vale yo les preguntaría a los trabajadores de cementos lemona

y les preguntaría a sus familias insisto unos en la pancarta otros mediando cada uno en su postura

fruto de su actuación esta reforma introduce una asimetría estamos absolutamente de acuerdo entre

producto de los recursos interpuestos pero por eso precisamente creemos que hace urgente el que las partes legítimas para cumplir acuerdos

a buscar un marco que permita establecer al menos unos mínimos para no entrar en una espiral de conflictividad que no sabemos dónde puede terminar

una conflictividad entre las partes mal canalizada puede llevar la situación

todavía mucho más preocupante que el hoy existente a un punto más preocupante precisamente para la parte más débil para los trabajadores y trabajadoras y también para las empresas porque una desregulación

por ello es urgente que se alcancen acuerdos de calado entre organizaciones sindicales y empresariales para seguir avanzando

de lo contrario la viabilidad de muchas empresas puede verse seriamente comprometida y no solamente la viabilidad de las empresas desde mi punto de vista la propia cohesión social en cuanto a los puntos más controvertidos de la reforma respecto a la negociación colectiva

el partido que sostiene este gobierno se pronunció en contra precisamente por la desregulación que supone

siendo coherentes con nuestra postura utilizando los instrumentos de los que disponemos y con el fin de coadyuvar a posibilitar un marco de acuerdo entre las partes desde el departamento de empleo y políticas sociales nos hemos propuesto actuar con los interlocutores sociales

ese marco de relaciones laborales como ya he dicho nuestro trabajo es el de ayudar o el de mediar como usted dice en la negociación

que se pueda producir desde el absoluto respeto a la autonomía de las partes y buscando siempre el consenso entre las mayorías

cuál es la mayoría sindical y reconociendo la mayoría de ambas partes este gobierno va a ejecutar la legislación laboral en aquello que le competa no podemos ser irrespetuosos con la ley eso sí sin permitir ninguna ingerencia por parte de la administración del estado

como otros por cierto señor matute no son irrespetuosos con la ley cuando gobiernan sino son a veces

en este sentido tenemos intención de crear si es posible de forma consensuada con los agentes sociales

que sirva para resolver los conflictos porque sino como usted mismo ha recordado estaríamos abocados a que esos conflictos se resuelvan en la comisión consultiva

donde por cierto algún sindicato que no quiere participar en los órganos de aquí sí tiene representación allí

que nos pueda permitir encajarlo en el actual diseño del propio consejo de relaciones laborales no hacer nada como se nos ha solicitado desde diferentes ámbitos políticos sindicales

porque de no hacerlo la resolución de los mismos recaerá en un órgano ajeno a esta comunidad en la que ya ha creado el estado llegar a acuerdos en esta materia también es construir un marco propio de relaciones laborales desde la crítica

al mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad con especiales dificultades

asimismo se preveía la supresión de la línea de subvenciones de ayudas a la inversión generadora de empleo para personas con discapacidad me refiero a los doce mil euros por la creación de cada contrato indefinido vinculado a cualquier inversión realizada por un centro

por ello le preguntamos cuál es el criterio de su departamento en torno al empleo protegido en euskadi a fin de mantener y garantizar el empleo de las personas con discapacidad

el compromiso de este departamento de empleo y políticas sociales por la promoción del empleo protegido es conocido y reiterado en más de una ocasión ante esta misma institución

es ajeno a las consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo

generalizados en todas las instituciones en muchas de ellas ha sido el de mantener las cantidades ejecutadas en el ejercicio pasado para el mismo fin para mantener el mismo número de empleos ese es el criterio

la misma dotación del año pasado para el mantenimiento de los empleos eskerrik asko aburto jauna

y son un modelo a seguir en el estado la forma de organizar su actividad económica las herramientas de inclusión laboral y el apoyo institucional son los referentes que han ayudado a que sea un patrimonio incuestionable de euskadi

y de las instituciones vascas por eso el grupo socialista nos inquieta y nos preocupa que la crisis económica sirva de excusa para eliminar o reducir incentivos

para mantener y garantizar los puestos de trabajo de los centros especiales de empleo

lógicamente tampoco han podido escapar de la crisis por eso señor consejero ahora más que nunca debemos considerar que los centros especiales de empleo no pueden financiarse

por lo que la participación pública es y seguirá siendo imprescindible para su viabilidad en definitiva debe constituir una obligación ineludible de su gobierno mantener y garantizar el empleo de las personas con discapacidad

debe ser una prioridad para la defensa del empleo de calidad de las personas con discapacidad señor consejero en este parlamento se aprobó una proposición no de ley en marzo del dos mil doce firmada por todos los grupos de la cámara

vascos relativo al empleo protegido en euskadi por la que entre otras medidas instaba al gobierno vasco a mantener y a actualizar las ayudas a los centros especiales de empleo

mediante una subvención del veinticinco por ciento del salario mínimo interprofesional destinada a contribuir a financiar el coste salarial correspondiente

y o grado de la misma se encuentran con especiales dificultades de inserción laboral nos quedaríamos menos preocupados si usted nos da garantías de que se va a mantener esta ayuda que permite a los centros especiales de empleo vuelvo a decir mantener y garantizar los puestos que ya tiene cuando hablo de las ayudas a los centros especiales de empleo

de los incentivos para el mantenimiento de empleo de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción

euros de los incentivos a las unidades de apoyo a la actividad profesional para los centros especiales de empleo cuatro coma cinco millónes de euros de los incentivos de empleo con apoyo a personas

y también de los incentivos a la inversión generadora de empleo para la creación de cada contrato indefinido vinculado a cualquier inversión realizada en los centros especiales de empleo

a fin de regular y consolidar los avances logrados en las últimas décadas

y en especial aquellas con más dificultades a finales del dos mil doce este borrador de decreto se encontraba en fase de instrucción y su aprobación resolvería estas cuestiones
vuelvo a repetir que nos quedaríamos muy tranquilos con que nos asegurase que los incentivos a los centros especiales de empleo se van a mantener muchas gracias eskerrik asko

globalmente el esfuerzo que vamos a realizar este año no es inferior al finalmente realizado en el año dos mil doce teniendo en cuenta que las disponibilidades presupuestarias son mucho menores en la convocatoria de centros especiales de empleo la línea de subvenciones destinada a la financiación del cincuenta por ciento

ejecutó un presupuesto de treinta millónes de euros la previsión de este año es de treinta millónes de euros la línea subvencional de inversiones generadoras de empleo en el año dos mil doce ochocientos mil euros esta partida sí ha sido eliminada este año porque donde hemos pretendido volcar nuestros esfuerzos es en el mantenimiento del empleo existente y no en la creación de nuevo a pesar de que

en la convocatoria de unidades de apoyo a la actividad profesional la

cuatro millónes de euros aquí incrementamos señora sarasua en la convocatoria para la ampliación transitoria de las subvenciones por el mantenimiento de empleo en los centros especiales de empleo

esta convocatoria solamente fue obligatoria hasta el año dos mil once en el año dos mil doce no se presupuestó nada porque ya no existía la obligatoriedad pero

en noviembre casi cuando estaba finalizando el año se creó una convocatoria con cinco millónes de euros que no alcanzó para pagar todas las solicitudes se realizó un prorrateo de manera que no se llegó a cubrir el setenta y cinco por ciento del salario mínimo

es decir cincuenta por ciento más veinticinco por ciento sino que se llegó al sesenta y uno por ciento este año como el anterior de entrada no se ha presupuestado cantidad alguna pero si hubiera posibilidades también a lo largo del año dotaríamos las cantidades

a la que se hace referencia también en la pregunta la solicitud se presentó en el año dos mil doce

porque justificaban la ayuda para el mantenimiento de personal funcionario situación

en el año dos mil doce presentaron la misma justificación pero por alguna razón que hoy desconocemos no se detectó esa situación por el gobierno anterior

le formulo la siguiente pregunta cuál es el criterio del gobierno en relación a las medidas a poner en marcha para abordar las consecuencias de la reforma laboral en materia de ultraactividad

aburto jauna zurea da hitza nuestro objetivo es que las partes

accedan a hablar negociar y acordar una solución en esta materia por ello llevamos desde el inicio de nuestro mandato empeñados en una labor de intermediación entre las partes porque como usted conoce el artículo ciento cuarenta y nueve punto uno punto siete de la constitución establece que el estado tiene competencia exclusiva

sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas eskerrik asko aburto jauna jarraian